espero se atreve a apoyar el mantenimiento de la central nuclear de garoña sin embargo

de los dos grandes partidos estatales la razón de la falta de soluciones a este problema

y vasca en su conjunto nos exige dar un paso más a todos los presentes hoy es el día de dar dicho paso la iniciativa que presenta euskal herria bildu no busca alargar el debate sobre garoña busca únicamente poner soluciones

ya de una vez por todas la reapertura y el mantenimiento de la actividad de la central nuclear de garoña central que permanece abierta únicamente por los intereses económicos de dos grandes empresas energéticas iberdrola y endesa

sobre la política energética de los diferentes gobiernos

multimillónarios voy a pasar a darles algunos de esos datos endesa ha tenido unos beneficios en los primeros nueve meses del año dos mil catorce

al presupuesto del gobierno vasco en la partida destinada al empleo y a las políticas sociales endesa ha realizado durante el año dos mil catorce el mayor reparto de beneficios jamás realizados en el estado español

millónes de euros cantidad que supera en más de trescientos millónes el presupuesto de dos mil quince de todo el gobierno vasco

un beneficio neto en dos mil catorce según datos recientes de dos mil trescientos veintiséis coma cinco millónes de euros lo cual es cinco veces más que el presupuesto del gobierno vasco para desarrollo económico

y mientras estas empresas ganan estas millónadas al año la factura que cada uno de nosotros y nosotras y toda la ciudadanía en su conjunto tiene que pagar ha subido un sesenta por ciento y todo se debe a que se está comercializando con un bien público estas dos empresas son las dueñas de garoña

la desinformación y el chantaje quieren mantener abierta la central de garoña para seguir aprovechándose de un mercado energético que les permite tener beneficios

ambas empresas están dispuestas a chantajear políticamente a los gobiernos para seguir llenando sus bolsillos de dinero y todo gracias a aquellos que permitieron y permiten una estafa cometida por el lobby energético que nos cuesta de euros a la ciudadanía los responsables de permitir esto son los que han gobernado de la mano de estas y de otras empresas del sector han creado un escenario en el que estas empresas cargan las facturas de la ciudadanía día a día semana a semana mes a mes

sus beneficios salen de nuestros bolsillos y quieren más quieren mantener abierta garoña para beneficiarse de las ventajas

y todo mientras hay familias que no pueden pagar la electricidad ni la calefacción de sus casas

el cierre de todas las centrales y apostamos por una reconversión de los sectores energéticos en base a las energías renovables recuperando este sector para lo público como estratégico que es para la ciudadanía y en base a las necesidades

con estos datos pretendemos situar las bases sobre el debate político que hay que acometer

por los intereses económicos de las dos empresas que están detrás de garoña

hemos pretendido salir de este pleno con el mayor consenso posible

a la historia de la central los puntos que hemos consensuados con el partido nacionalista vasco y con el partido socialista de euskadi son los siguientes el parlamento impugnar directamente cualquier acto o disposición administrativa que pueda suponer la reapertura de la central nuclear de garoña dicha impugnación se fundamentará

que establece las bases para la gestión responsable del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos no se ajusta derecho el parlamento insta al gobierno vasco

que cree un comité científico de expertos para analizar las consecuencias en el ámbito de la seguridad energético y medioambiental que puedan derivarse

las funciones específicas y la composición del citado comité se acordarán en una comisión conjunta formada por las comisiones de desarrollo económico y medioambiente

el amparo de la comisión europea ante una posible reapertura de la central nuclear de garoña para que supervise el procedimiento de concesión de una hipotética licencia de apertura de la mencionada central impidiendo el incumplimiento de las exigencias de seguridad impuestas después del accidente de fukushima ante la posibilidad de concesión de una nueva licencia

estos tres puntos son básicos para alcanzar un punto de no retorno en relación a garoña

de la política de las palabras a la política de los hechos consumados es hora de acabar con las presiones que acometen las empresas energéticas sobre el poder político es hora por ello de acabar con las relaciones existentes entre los grandes partidos políticos

con las empresas energéticas hay que poner fin a las puertas giratorias hay que poner fin a que personajes como acebes este año gane uno millón de euros

hay que poner fin a esta política y al enriquecimiento de aquellos que han legislado para y por los lobbies energéticos es momento de la política sincera y sin debes en nuestros balances la sociedad vasca estoy seguro que la de fuera de euskal herria también así lo secundarán el próximo día veintiocho

es momento de volver a llenar las calles exigiendo una vez más el cierre de la central y esperemos que por fin sea la última garoña itxi orain

salgo a esta tribuna para hacerlo qué se pretende

esta proposición no de ley sobre garoña hay dos opciones la primera es debatir sobre lo debatido una y otra vez

que tiene que tener garoña y con algunos en función de la actualidad de cada momento

lo dicho esa es la primera posibilidad pero no es la posibilidad por la que ustedes traen este debate hoy aquí hay otra posibilidad

vamos a ver si el pp aguanta el tipo vamos a traer un texto más duro un texto más difícil un texto

de las que luego hablaré vamos a ver si esa foto que algunos tanto les molestó

hasta aquí hemos llegado con garoña hoy se repite o no se repite en este parlamento

es para eso no para repetir y debatir sobre lo malo que es garoña

para eso no traemos esta proposición no de ley es para lo segundo para ver si el pp aguanta el tipo hoy aquí en el parlamento vasco

de este texto y lo vamos a hacer porque a pesar de que no estamos de acuerdo

no van a sacarnos de nuestra posición de coherencia una vez tomada de decir a quien haya que decir donde haya que decir debe cerrarse que es un peligro para la seguridad y que además la oposición mayoritaria en nuestra ciudad aquí en la capital del país vasco en vitoria y también en el conjunto de euskadi esa oposición mayoritaria dice que hay que cerrar garoña

no de ley no va a salir adelante o mejor vamos a cambiarla hoy para decir otra vez todos juntos

garoñarik ez la prueba de que lo que se proponía hoy aquí y lo que se pretendía hoy aquí era

sobre garoña sino a ver si en esta ocasión dejamos al pp fuera a ver si conseguimos buscar alguna fisura en todo esto son las palabras del portavoz que me ha precedido

al mayor consenso posible el de toda la cámara el grupo nacionalista el grupo socialista y bildu oiga ni un segundo el intentarlo con el grupo popular

vamos a decir hoy aquí con nuestros votos no a garoña de nuevo como hicimos la otra vez ahora bien también me van a permitir que diga

en las que no se puede estar de acuerdo en general porque

de a veces rizar el rizo o llamar a las cosas de otra manera para poder volver a traer un debate a esta cámara en fin el todo vale creo que no vale

no es útil yo me preguntaba en el primero de los puntos en el que se dice vamos a impugnar cualquier cosa vamos a impugnar todo

absolutamente todo lo que diga que signifique cualquier posibilidad de reapertura de garoña yo me preguntaba ahora tomando alguna nota en el escaño digo y si mañana

garoñarik ez no se puede decir más claro ahora si mañana hay una decisión del parlamento del congreso de los diputados con las mayorías que sea con este gobierno o con otro para acometer el plan de inversiones necesarias para garantizar la seguridad de garoña un plan de inversión para garantizar medidas de seguridad no debe cambiar nuestra posición del cierre de garoña pero vamos a impugnar una decisión tomada en el presupuesto

que nos afecta ustedes piden hoy esto se dan cuenta de que puede ser una de las medidas que vamos a impugnar vamos a impugnar por ejemplo una medida de inversión para mejorar las garantías de seguridad aunque no estemos de acuerdo con que la central esté abierta impugnaríamos desde este parlamento una decisión así ustedes lo están pidiendo hasta ese grado

e insisto eso no quita para que toda esta cámara y el partido popular del país vasco el primero digamos a todos

hasta el último de los afectados que pedimos el cierre de esta central de garoña

se decide realizar un plan de empleo especial en la zona con personas afectadas en el entorno

son preguntas que dejo sobre la mesa no busco respuestas tampoco pretendo realizar ningún debate que provoque a ningún grupo porque insisto

garoñarik ez el grupo popular vasco está en este asunto y lo siento no van a conseguir separarnos

va a votar con la cámara para decir no a garoña y a todos los que defienden su continuidad sea quien sea pero naturalmente también lo que queremos dejar claro es que hay algunas cuestiones que se plantean que creo que no son de sentido común si el texto dijera

el parlamento vasco insta a que se analice las decisiones y en su caso se tomen las decisiones judiciales pues podríamos entenderlo

impugnamos todo de entrada y sin saber sin conocer sin preguntar todo no pues es una decisión que nos sorprende decía también el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra que no queremos centrales ni cerca ni lejos

no tengo mucha vía en este parlamento pero no sé cuántas iniciativas de su grupo o de cualquier otro para que en francia

la asamblea francesa o al parlamento europeo no sé cuántas iniciativas hay

es una en función de diferentes opiniones pero hay otras entonces yo entiendo el discurso de

pero la coherencia lo que da coherencia a los discursos es ser coherente hasta el último momento

muchos años antes y después con unos y con otros coherencia pero claro yo también votaría la misma resolución si fuera para instar a la asamblea

que la central de garoña no me voy a extender mucho más

nuestra posición hoy como grupo popular va a ser refrendar la decisión que tomamos en esta cámara con el apoyo de todo el grupo popular a decir para todo el que tiene que escucharnos que el partido popular en el país vasco no está de acuerdo con la reapertura

lo tiene que escuchar el grupo popular no quiere dejar ambages por eso

ue me consta que no nos la permitirían seguramente ni entrar en matices

de esta manera sí o de esta manera no vamos al fondo de la cuestión hoy el grupo popular va a respaldar esta transacción de tres grupos de la cámara para hacerlo

unánime para que el mensaje sea claro el parlamento vasco en esto no tiene fisuras vamos a decir garoñarik ez lo vamos a decir todos y lo vamos a decir juntos otra vez

en esta ocasión ha costado llegar aquí a este parlamento ha habido muchas ocasiones en las que hemos hablado de garoña pero en esta ocasión

en un pleno del parlamento o no como consecuencia de alguna opinión en la que se planteaba que

y me temo que de momento por lo menos tendrá que tratarse en algunas más porque el problema no es cuántas veces se ha tratado en este parlamento

y esa amenaza de reapertura de la central choca con lo que es la posición política n estos momentos unánime de este parlamento socialmente de la inmensa mayoría me dice el señor maneiro que unánime no efectivamente setenta y cuatro uno

en la sociedad hay también una mayoría

posición política bastante avanzada de que la energía nuclear es una energía que hay que ir paulatinamente

la energía nuclear es una opción la energía nuclear ha tenido su vida ha tenido su historia nosotros hemos contribuido a ella hemos pagado por tenerla cerca bueno pues el riesgo de haber convivido con ella

ya ha expirado su vida útil ya el gobierno anterior el gobierno anterior al gobierno del partido popular el gobierno socialista dejó cerrada esa central

de esa central nuclear que después con planteamientos que alguno de ellos describiré ha intentado

por lo tanto aquí hoy no venimos a debatir este asunto y a tomar una posición porque tengamos ganas de ver si el partido popular

sino lo que tenemos ganas es de aguantar el tipo nosotros es decir de aguantar el tipo de la seguridad el tipo de las energías modernas de las energías renovables de las energías

a la energía nuclear por la que venimos trabajando durante mucho tiempo y si

en mantener la energía nuclear si no estuviera empecinado

la idea de la reapertura de la central nuclear de santa maría de garoña obviamente no estaríamos aquí por lo tanto la solución está en ustedes mismos no hagan

que nos escuche quien nos tenga que escuchar porque décimos alto y claro que no estamos de acuerdo con la reapertura de la central y por otro lado como que hay un acoso hacia ustedes la verdad que no es tan importante el partido popular en el sentido del debate en todo caso es importante el gobierno de españa

bastante poco explicables y bastante poco presentables mire el gobierno de españa ha convertido la reapertura de la central nuclear de santa maría de garoña en un problema

de soberbia en un problema de chulería en un asunto de ordeno mando y hago saber porque

fuera una opción política la energía nuclear y que el gobierno anterior dejara las bases puestas para su cierre en realidad quien dice que no quiere seguir explotándola es

es un mérito de la política si se quiere decir así sino que es el propio nuclenor el que dice oiga no me es rentable y no me es rentable porque si yo tengo que pagar la fiscalidad que ustedes pusieron

aunque todavía no lo han explicado si además tengo que invertir en la seguridad

pues esto no me dan los números y como no estoy dispuesto a invertir

o en hacer medidas de seguridad yo voy a proceder a su cierre pero de esa realidad económica por la que nuclenor dice voy a cerrar la central nuclear de santa maría de garoña hay un gobierno del partido popular hay un gobierno que

vulnera sus propios compromisos pone una fiscalidad y parece que la quita sabe que tiene que cumplir con una seguridad y se la salta fuerza al consejo de seguridad nuclear

se posicione sobre la posibilidad de reabrir todo esto se arrastra ante nuclenor implorándole de que tiene que plantear

la central nuclear cuando ellos no le ven ninguna rentabilidad se supone que además en ese arrastre hay una serie de planteamientos de compromiso económico con el propio nuclenor porque si no las cuentas no salen y este es el problema el problema es que

han hecho un símbolo de esto es decir una central nuclear si el partido popular

no autoriza su cierre no podrá ser posible su cierre y si incluso por encima de la política

y nuclenor quiere cerrarla nosotros también haremos lo imposible y jugaremos las bazas que hagan falta para que nuclenor tenga que torcer el brazo y tenga que proceder a la reapertura

esto es lo que está ocurriendo en este momento y esto es por lo que estamos aquí por intentar evitar que se consume ese acto de soberbia ese conjunto de atropellos sobre la fiscalidad sobre la seguridad sobre la confrontación que implica esa decisión con las instituciones y con el conjunto de la ciudadanía

en esa decisión del gobierno de españa no hay razón no hay progreso no hay seguridad

no hay absolutamente nada es decir nadie quiere esa energía aquí nadie la quiere pero es que no es que nadie la quiera es que nadie la necesita es que no es necesaria

la central nuclear de santa maría de garoña por consecuencias económicas de nuclenor llevamos tiempo llevamos meses muchísimos meses y no se ha resentido nada

sigue habiendo abastecimiento de energía suficiente para las necesidades que antes suministraba la central nuclear no hay ninguna nueva situación no hay ninguna nueva orientación de demanda de necesidad de exigencia

pero ustedes se empeñan en seguir en la idea de la reapertura

es un acto de soberbia es un acto de confrontación con las instituciones y con la ciudadanía es un intento d imponer algo que en estos momentos

superado pero este es el problema de la política que hace su gobierno señor maroto y yo entiendo su incomodidad porque usted ha hecho un proceso y su partido en el país vasco ha hecho un proceso ese proceso ha pasado de ser no hace mucho tiempo muy pronucleares a poco a poco ir abandonando ese terreno y al final decir por las circunstancias que sea que

que les dice que sí que pase lo que pase tiran adelante yo entiendo esa incomodidad pero bueno no se revuelva usted contra las iniciativas políticas como muy narcisista sobre el ombligo del mundo

y si el partido popular estuviera aquí en el país vasco o en esta cámara de hocicos con la reapertura de la central

sea es más el texto si ustedes estaban de acuerdo con lo anterior ustedes pueden perfectamente suscribir este texto porque este texto en relación con el anterior tiene

la primera que además del parlamento se insta al gobierno vasco a que actúe cuando haya elementos para proteger el que no se haga la reapertura de la central nuclear de santa maría de garoña este es el primer punto

ni es venir aquí en fin ya sabe usted esto de la teoría política puede venir con planteamientos absurdos tratar de reducir al absurdo las cosas qué satisfecha me he quedado porque tengo razón es reducir al absurdo esto tampoco es un ejercicio intelectual muy brillante reducir las

estamos hablando de pedir el amparo de la comisión europea para que no facilite

una situación de estas cuando ya es totalmente inviable esta central en el aspecto económico y en el aspecto de la seguridad estamos pidiendo que haya un comité de expertos que además abunden más en la materia y expliquen mejor del porqué de lo nocivo de la posibilidad de la reapertura

esto usted no lo puede marear ni darle mucha vueltas

de primero aquí estoy he renacido acabo de llegar me he caído del caballo

encima que la estoy pidiendo encima que soy el último en llegar es que ustedes además

que igual a mi gobierno no le gusta o que pueden incomodar al partido popular oiga mire las servidumbres de la política desde luego levantar una pared y que no te caiga el polvo es un poco difícil claro ustedes

o a ayudar a levantar la pared en el último minuto y efectivamente es más difícil más complicado y crea más problemas

en fin no hay gran diferencia entre lo anterior y lo actual lo que hay es de nuevo una posición de este parlamento que me alegro mucho de que sea

lo que quiere hacer el gobierno de españa y por lo tanto todo lo que esté a nuestro alcance

es el compromiso político de este parlamento y la instancia que hace a nuestro gobierno eskerrik asko prieto jauna mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

volvemos a hablar de la central nuclear de garoña y yo volveré a repetir los mismos argumentos que he planteado en otras ocasiones creo que sí se puede decir que upyd

en relación a esta cuestión defendemos lo mismo aquí

y con los mismos argumentos además lo que no me parece razonable es que haya un representante político

va a votar a favor de una iniciativa porque tiene el apoyo de la mayoría de la sociedad eso me parece

más grande que se puede escuchar en un representante político en este caso del señor maroto usted vota porque hay una mayoría de la sociedad

tendrá que votar a favor de esto si usted cree que efectivamente lo que aquí se propone es razonable porque si no para qué están los partidos políticos habría un solo partido político en euskadi

en base a encuestas en base a demoscopia nosotros no creemos en eso nosotros creemos en los argumentos en las ideas pensamos que hay que defender una determinada cosa la defendemos aunque nos quedemos solos no tenemos ningún problema por lo tanto yo creo que aquí hay tres asuntos a debate otra vez o sobre los que yo quiero hablar como lo he hecho en otras ocasiones por un lado el debate sobre la energía nuclear y aquí sería interesante saber

en relación a la energía nuclear y también la posición del partido nacionalista vasco en relación a la energía nuclear saber cuál es su posición si es que tiene alguna

finalmente algo sobre lo que también hemos tratado que es el vodevil al que hemos asistido durante los últimos años y que hemos venido denunciando respecto al debate sobre la energía nuclear nosotros pensamos que en españa se ha venido haciendo mucha demagogia con todo lo relacionado con la energía nuclear

sin argumentos contrastados sin datos con medias verdades o incluso con falsedades sin ir más lejos ha habido quien ha dicho en este parlamento que la central nuclear de garoña

con las renovables como si estas pudieran constituir el único componente del mix energético necesario todavía recuerdo las palabras del señor ramírez escudero en junio de dos mil catorce cuando hablaba de la oxidada central nuclear o cuando decía que no es justo que se ponga en peligro la vida de trescientos mil personas

ni siquiera imaginar las consecuencias de un accidente nuclear en garoña o cuando centraba se refería y nombraba a las centrales de chernóbil y fukushima o cuando decía que una hipotética nube tóxica de garoña se presentaría en la calle dato en apenas dos horas y se preguntaba quién podría evacuar una ciudad como vitoria en dos horas

estos son excesos verbales que no llevan a ningún sitio hoy también el señor maroto ha dicho que la central nuclear de garoña es un peligro entonces cuando alguien dice que la central nuclear de garoña es un peligro para la sociedad creo que tiene que aportar datos muy concretos que lo demuestren y si no concreta esos datos

que se inventa esa argumentación o que directamente miente

semejantes expresiones es un exceso sobre todo cuando quien los utiliza no aporta documentación

pura demagogia por cierto la señora tapia aclaró en noviembre de dos mil catorce que la parada temporal o cierre de la central nuclear de garoña se debió a motivos la central está parada y está parada por razones económicas no por razones de seguridad nosotros pensamos como la consejera tapia que en el actual mix energético la energía nuclear juega un papel importante y que sigue siendo por tanto necesaria nos gustaría conocer cuál es la posición en relación a esta cuestión tanto del partido nacionalista vasco como del partido popular si considera que la energía nuclear es a día de hoy necesaria nosotros pensamos que sí y por lo tanto lo que décimos

es a día de hoy necesaria deben mantenerse las centrales nucleares que están abiertas o estudiarse la posibilidad de reabrir garoña eso sí en el caso

establecidos de seguridad todos y cada uno de ellos y si no cumple evidentemente no puede reabrirse y otra cosa evidente también es el vodevil al que hemos asistido durante los últimos años y que seguramente sea lo peor de este asunto lo voy a resumir pero creo que tiene

nuclenor pide formalmente el cierre de la central nuclear de garoña y avisa de que si se produjesen cambios normativos que así lo permitiesen consideraría la posibilidad de solicitar

nosotros decíamos por aquellos días que da la sensación de que nuclenor ha tratado de presionar al gobierno para poder disfrutar de determinados beneficios y privilegios por eso defendimos alguna enmienda que trataba de decir al gobierno usted no ceda a las presiones y actúe teniendo en cuenta el interés general

en cuyo segundo punto proponíamos instar al gobierno de españa a no crear normativa ad hoc para ninguna central nuclear

ni a realizar interpretaciones tramposas de la normativa vigente para beneficiar determinados intereses particulares ni a conceder ningún tipo de beneficio fiscal personalizado

chantaje o amenaza y actuar siempre y en particular en este asunto con absoluta claridad y transparencia que es algo que finalmente desde luego no ha hecho

que permitiría a la central de garoña solicitar la renovación de su licencia y su posible reapertura antes del día seis

ad hoc además el partido popular suprimió

nucleares al eliminar su retroactividad además de permitirles no pagar dicho impuesto mientras la central esté cerrada es decir se hizo lo que upyd

se creó normativa ad hoc para permitir su reapertura y a nosotros esto obviamente no nos puede parecer serio todo lo contrario nos parece un vodevil es decir el gobierno hizo lo que nosotros no queríamos que hiciera incumplió digamos esa enmienda que nosotros habíamos presentado porque sospechábamos que el gobierno iba a actuar de ese modo después

para que permanezcan operativas los próximos diecisiete años es decir hasta el dos de marzo

el comunicado de nuclenor incluía el compromiso de la central de acometer

por el consejo de seguridad nuclear con anterioridad relativas al aislamiento de contención la independencia de sistemas eléctricos protección contra incendios

reserva nuclenor remitió el pasado treinta de septiembre al consejo de seguridad nuclear la planificación de las actividades previstas para dar cumplimiento a las exigencias que se le hacen

una serie de requisitos adicionales que por lo tanto debe cumplir y que estarían valoradas en aproximadamente ciento cincuenta millónes de euros

nuestra enmienda qué es lo que dice nuestra enmienda proponemos instar al gobierno de españa a mantener

y por tanto todas las inversiones necesarias como condición indispensable para que la central nuclear de garoña pudiera si fuera el caso reiniciar su actividad paralizada haciendo respetar en todo caso y sin trampas de ningún tipo la normativa europea de seguridad y las exigencias internacionales por lo tanto que pueda reabrirse llegado el caso siempre y cuando

y si no las cumple debe cerrarse definitivamente esto es lo que nosotros defendemos que creo que podría incluso apoyarlo una mayoría de parlamentarios de esta cámara de sentido común puesto que hay varios grupos en esta cámara creo que consideran que la central o la energía nuclear es a día de hoy todavía indispensable en fin eso es por lo tanto lo que proponemos por eso mantenemos nuestra enmienda y es la que nosotros vamos a votar el señor maroto

en su intervención desea que la central nuclear de garoña es un peligro

señor maroto tiene usted que demostrar que la central nuclear de garoña

se puede decir que no es necesaria en fin todas las posiciones políticas son respetables pero si alguien dice que es un peligro que se cae a pedazos o que hay riesgo inminente de nube tóxica me imagino que tendrá que dar argumentos

al grupo popular están ustedes de acuerdo con que la energía nuclear a día de hoy es indispensable si la central nuclear de garoña

establecidos de seguridad todos y cada uno de ellos ustedes estarían de acuerdo en que

reabrirse en fin espero que el señor maroto me conteste por otro lado yo creo que de tanto insistir en que el grupo popular está perfectamente cohesionado en relación a esta cuestión y que todos piensan exactamente lo mismo

creo que nos da la sensación a más de uno que es justo lo contrario por supuesto cada partido político tiene

a cualquier cuestión pero en este caso yo creo que surgen dudas sobre la coherencia del partido popular porque defiende aquí una cosa y otra cosa la defiende en el resto de españa e incluso los argumentos planteados hoy aquí a mí al menos
no me han parecido en absoluto convincentes amaitu mesedez maneiro jauna por lo tanto para concluir

es indispensable es así es un hecho en el futuro puede que no pero a día de hoy es indispensable y por lo tanto la central nuclear de garoña en el caso de que cumpliera todos los requisitos establecidos podría reabrirse garantizando por supuesto

somos conscientes de que la moción que traemos hoy no es una moción ni emocionante ni ilusionante pero sin embargo es una moción necesaria han pasado ocho meses desde que el parlamento vasco en junio del pasado año aprobara una moción similar

de la empresa explotadora de garoña silencio de las dos eléctricas que mantienen el cincuenta por ciento cada una de dicha empresa silencio del ministro de industria silencio del consejo superior de seguridad nuclear

del gobierno de madrid y quienes vivimos cerca de garoña sabemos que evidentemente se están manteniendo las instalaciones

muy poco tiempo después de que una hipotética decisión de reapertura de dicha central por eso insistimos en

bildu esta moción nosotros vimos la ventaja de volver a repetir otra vez en la mayoría

lo cual puede ser una especia como de llamada de atención de aldabonazo

para que sepan que aunque han pasado ocho meses de desinformación nuclear todavía el parlamento vasco continúa diciendo que no a garoña lo haremos el sábado veintiocho en las calles de gasteiz

y por eso reconozco que no es una moción de una calidad insuperable pero es una moción que era necesaria por el tiempo que ha pasado sin tener ninguna noticia sobre ella el tercer punto de la moción pues es el solicitar el amparo de la comisión europea en el caso de que se volviera a reabrir un

el segundo punto habla de crear un comité científico que tampoco tendría una validez ejecutiva absolutamente para nada pero también es una buena idea aunque evidentemente en la práctica no tenga mucho recorrido y la primera también es una medida jurídica que puede ser un brindis jurídico al sol porque hay juristas que dicen que aunque el parlamento que dudan de que el parlamento podría impugnar cualquier exposición administrativa de madrid pero incluso aunque se pudiera impugnar dudan que

dicha impugnación es decir que reconocemos nosotros los que hemos firmado yo al menos reconocemos que la ventaja de esta moción de hoy

de garoña la ventaja de esta moción es la cantidad de votos

la calidad que se propone que evidentemente no varía mucho más

en la justificación que incluía bildu antes de la moción en dicha justificación se hablaba de que el motivo de esta moción era que las explicaciones de arantza tapia

no fueron suficientes nosotros pensamos que sí fueron suficientes y pensamos también que este gobierno vasco y que este parlamento vasco han hecho todo lo que tenían que hacer y todo lo que podían hacer en el tema de garoña es una obviedad recordar que garoña está en burgos que burgos pertenece a castilla y león y castilla y león es españa y que sabemos que quien cierre garoña

con esas medidas pensamos que el gobierno vasco ha hecho lo que tenía que hacer y también que la información que dio arantza tapia

veraz que es la que tenía que haber dado respecto al señor maroto yo creo que su primera parte de intervención ha sido

del enemigo y que todos iban a por él le puedo decir que es absoluta y completamente falso en las negociaciones que hemos tenido

nunca se ha hablado del pp solo se habló de la moción esta moción es una moción anti garoña no es una moción anti pp

frases que la foto del pp molestó mucho la foto de junio cuando el pp en el país vasco por fin decisión de votar en contra de la reapertura de garoña yo lo quiero decir que por nuestra parte nos agradó

sesenta y cuatro votos en el parlamento ya somos setenta y cuatro es decir que ese complejo que tiene de que esta moción es anti pp es radical y completamente

nadie cuando estábamos negociando la moción pensó en vamos a hacer esto

si no se lo diría lo contrario absolutamente nadie se acordó de ustedes

que puse de la nube tóxica parece que le ha gustado pero señor maneiro tengo que recordarle que es una cosa

en ese caso pero si usted mide la distancia entre garoña y vitoria en kilómetros evidentemente

hasta este parlamento y si no pregúnteselo a los habitantes de fukushima y de chernobil a los que habitaban a varias decenas de kilómetros a ver si la nube tóxica es verdad o no es verdad también decía usted que el problema de garoña no es económico y eso también es inexacto

es inexacto porque ese problema económico deriva de las grandes inversiones que hay que hacer en seguridad es decir primero está el problema de la seguridad luego como es un problema económicamente una inversión muy fuerte eso es lo que hace dudar de la rentabilidad de la explotación pero la inversión fuerte hay que hacerla

la seguridad no la economía como usted ha dicho en resumen que es una moción necesaria que teníamos que hacerla y que aunque sea repetir un poquito lo de ocho meses

a convertirse en algo cómico y sobre todo teniendo en cuenta que la coherencia en relación a las empresas energéticas no se situá en la votación que hoy pueda llevar a cabo aquí sino que se situá en los consejos de administración de dichas empresas no creo que sea un motivo de discusión ni para perder un segundo en él sí que me

le gustaría saber a toda la mayoría social que está en contra de garoña

si el alcalde si el máximo representante político de la ciudad va a participar en la manifestación del próximo veintiocho de febrero en gazteiz porque la postura de euskal herria bildu durante todas estos ha sido la misma hemos votado siempre exactamente lo mismo siempre nos hemos mantenido en contra de las centrales nucleares y lo haremos aquí y en la china popular

a las pruebas me remito lo decía el primer turno creo que del señor xabi prieto corríjame señor prieto si me equivoco he cogido sic ustedes

se empecinan en seguir defendiendo la reapertura de garoña si uno

que van a sacar al partido popular del país vasco de esta mayoría

yo no tengo ningún problema en decirle que no solo no me empecino

para evitar sorpresas cuál iba a ser la posición de nuestro grupo sí me ha sorprendido la posición

la interpretación que hace usted en relación a mi incomodidad al respecto de este asunto

señor prieto para decirle que a veces se está mejor incómodo que a veces

ponerse de lado y estar en la corriente

no es mi manera de ser y creo que para lo bueno y para lo malo con los aciertos y con los errores que eso puede llevar a cabo

el último en hablar de esto yo me remito ya que ustedes personalizan

la posición en relación al cierre de garoña siendo incómoda en todas las ocasiones la he defendido cuando era miembro de la oposición en el ayuntamiento y el presidente del gobierno era el señor zapatero la he defendido cuando era alcalde de la ciudad

la he defendido cuando era alcalde de la ciudad y el presidente era el señor rajoy y la ha defendido siempre por coherencia

en la política no es un problema es una ventaja si uno defiende

y no pretendo ningún protagonismo mas allá de decir que esto

de sus representantes públicos no ponerse en la ola ni en la vela de nadie sino defender lo que uno cree honestamente desde su convicción con aciertos y con errores

seguramente si repasa el acta lo digo porque son ustedes los que

en su caso concreto señor ramírez escudero recordará cuando

de garoña usted también fue el portavoz de su grupo y es absolutamente correcto que eso sea así y le recuerdo lo que usted dijo

usted dijo lo siguiente no hemos venido aquí a ver lo que hace el partido popular del país vasco hemos venido aquí a ver lo que hace maroto

se acuerda está en las actas de este parlamento claro que les lleva

hoy esa posición es una posición que comparte con el resto de la cámara

lo que estamos diciendo hoy no estamos de acuerdo con la reapertura de garoña también por una oposición de coherencia para no ponerse con la ola que va muy bien décimos oiga algunas cosas de las que ustedes traen

no son coherentes porque pretender tumbar todo ue es lo que dice aquí e impugnar todo lo que sea hablar de garoña

si mañana una moción o una ley por unanimidad en el congreso de los diputados

para continuar este parlamento se vería en la

aunque mantengamos nuestra posición contraria a garoña se dan cuenta de que eso es incongruente solo busca explicar lo que es de sentido común

en esto y por eso de forma muy educada y correcta

vamos a ver si conseguimos los mayores votos sí porque el pp vasco va a estar aquí vamos a decirlo claro es incómodo pero para mí mucho y para mi grupo también para otros portavoces que han

pero eso es lo que tiene la coherencia y lo vamos a hacer

y lo vamos a hacer por convicción y lo vamos a hacer por coherencia

llegan tarde mire en este asunto de las manifestaciones por garoña

yo como alcalde de vitoria en el ayuntamiento de vitoria he organizado en vitoria una concentración y una manifestación en rechazo a garoña ya la he organizado y la organicé yo como alcalde de vitoria por tanto en fin en ocasiones dar lecciones

en aquella manifestación que organicé yo en contra de garoña en esta ciudad había algunos creo que eran también ustedes los que estaban esperándome con un cartel que ponía maroto no sé qué o contra el pp no se quería que fuera

por convicción yo como alcalde de vitoria organicé en esta ciudad a pesar de todo una concentración contra garoña esa concentración se produjo y el mensaje fue contundente yo me sumo a este mensaje por convicción y por coherencia
amaitzen joan en este asunto en la política desde el primer día pese a quien pese y pase

presidenta una cosa para el señor maneiro y luego para el señor maroto señor maneiro

energía nuclear es indispensable yo no sé si está haciendo esta referencia a nivel general a nivel de españa desde luego de euskadi que es de lo que estamos hablando garoña que es de lo que estamos hablando en lo que significa garoña no es indispensable y la mejor demostración es que no funciona

sigue exactamente igual por lo tanto no es necesaria no es indispensable nadie la pide nadie la quiere y por eso hay que proceder al cierre

reapertura mire señor maroto usted tiene un problema de ego que es tremendo se ha dedicado diez minutos antes y cinco minutos después en la réplica quince minutos diciendo yo yo yo

en fin vayamos al fundamento político porque claro si usted

de lo que estamos tratando probablemente la posición política de su partido tendría la de aquí la del país vasco tendría más fundamento tendría más fuerza tendría más solemnidad con el yo yo yo en realidad da la impresión de que es de que es un ejercicio de publicidad de autopublicidad en fin hable del fondo del asunto si usted está en contra de

y cuando yo he manifestado y me he referido al partido popular y su cerrazón y en todo esto en relación con el sostenimiento de la central nuclear

la decisión no la tiene usted no es el partido popular del país vasco el que puede resolver este problema es el gobierno de españa es un acto de gobierno

está el señor rajoy está el señor soria y a ellos hay que responsabilizar obviamente por mucho que usted haga aquí ahora este equilibrio o esta brecha dentro del partido popular federal diciendo bueno que todo españa esté a favor de la central nuclear

yo creo que si rebajara un poquito el tono del ego probablemente esa posición tendría como mucha más credibilidad mire hay un libro que

digo se le atribuye porque hay versiones sobre si de verdad es de él o no

que se lo voy a leer que dice no ha de pellizcar ni golpear a su vecino de mesa

no ha de hacer ruidos de bufidos ni dar codazos ni poner caras horribles ni los ojos en blanco ni escupir ni prender fuego al compañero durante la comida ni poner la cabeza sobre el plato ni sentarse bajo la mesa comportándose en política

no tenga luego el problema de que se le sacude es decir si usted viene aquí y defiende la posición política de verdad pues probablemente todos tendremos una mayor sintonía o un mayor acercamiento porque en definitiva aquí estamos por la política y no por las siglas

a tener comportamientos que no son presentables que son egocéntricos hasta más no poder y viene con el yo

yo respeto que usted considere que esta central nuclear de garoña no es necesaria a día de hoy y que por lo tanto su reapertura no tiene sentido bien lo comprendo lo respeto e incluso puede que usted tenga razón el asunto es que grupos parlamentarios que están lanzando la idea en los últimos tiempos de que esta central nuclear de garoña se cae a pedazos y que en caso de que pueda reabrirse va a haber una nube tóxica sobre vitoria y a nosotros esto nos parece inaceptable que haya representantes políticos que vengan repitiendo esto

si se dan argumentos para decir que efectivamente esta central en concreto no es necesaria bien pueden respetarse e incluso usted en este caso puede tener razón

o que es un peligro me imagino que habrá que presentar pruebas o los estudios pertinentes sobre la cuestión y esto es lo que yo básicamente he venido a decir

nubes tóxicas de ahí nuestra enmienda que dice que se pueda reabrir en el caso de que se cumplan todas las condiciones establecidas de seguridad y si no se cumplen

creo que esto es lo más sensato y lo más razonable en relación al señor maroto en fin no sé si se siente cómodo si no se siente cómodo si se siente incómodo no lo tengo al final claro cómo se siente usted yo me siento cómodo

es decir cuando soy coherente me siento cómodo aunque esté en minoría no me queda claro cómo se siente usted a día de hoy y si se siente cómodo o incómodo

que se pueden sentir incómodos y que no entienden en absoluto su postura concreta esa es la sensación

no plantea ni un solo argumento de peso usted plantea esta posición porque considera que es la posición política que le va a dar más votos de hecho esa es su forma de actividad política habitual es decir usted señor maroto defiende una cosa o la contraria

de temas y lo hace en concreto con este asunto yo me siento cómodo yo soy coherente y yo defiendo las ideas en las que creo aunque me quede solo usted no y además le he preguntado si tiene datos en relación a la seguridad

y no me ha respondido y le he preguntado si el partido popular defiende la energía nuclear o no y tampoco me ha respondido

y tampoco me la ha contestado que se me conteste si efectivamente estos grupos en concreto consideran que la energía nuclear es necesaria o no yo creo que sí es posible que en el futuro no seguramente no a día de hoy sí a día de hoy sí estamos de acuerdo por lo tanto el señor oyarzabal la consejera tapia y un servidor ya somos tres algo es algo pero bueno estaría bien que

también lo digan y en todo caso señor maroto insisto en el caso de que esta central cumplieran todas las condiciones de seguridad en ese caso usted que diría

para ponerla no en funcionamiento sino para adecuar todas

más de ciento cincuenta millónes de euros de ahí el problema económico del que yo hablaba

si se quieren tomar esas medidas y se toman todas las medidas de seguridad nosotros vemos razonable que pueda

nuestro planteamiento coherencia y comodidad absoluta defiendo las ideas en las que creo aunque me quede solo como en alguna otra ocasión

señor voy maneiro voy a patentar lo de la nube tóxica porque lo utiliza usted más que yo todavía

de que garoña está mal pero también le podríamos hacer la pregunta por pasiva

de que garoña está bien porque si está parada por una parada técnica hace más de un año

no pida tantas pruebas de que está mal y aporte alguna de que está bien si es que las tiene

al final a convertir en un debate en lugar de garoña sí garoña no qué piensa el señor maroto de garoña y ninguno de los firmantes de la moción

ni esa intención yo le dije señor maroto la comodidad suya de su partido es una cosa personal no nos importa y es un problema suyo y de su partido

algo así como que iba a decir el señor maroto no fue por curiosidad o por intentar que el pp se posicionara fue por una cosa mucho más sencilla que usted puede que se olvide y que se la recuerdo

cuan do se votó garoña sí garoña no el pp contabilizó nueve votos a favor de la reapertura de garoña usted se fue o al servicio

qué votará usted no porque me interesara su voto particular sino porque en la votación anterior

por la única que yo le dije oiga por favor quédese aquí y vote para que sepamos qué dice maroto

pues puede que le deje más triste que alegre que en toda la negociación de la moción en ningún momento se ha hablado ni de usted ni del pp era una moción anti garoña y no era en ningún momento una moción anti pp se lo puedo asegurar y lo puede asegurar también el señor prieto

el orden del día se me había planteado la posibilidad de que se debatiera aparte de ese el punto número seis en lugar de este punto no sé qué ha ocurrido podemos debatir este yo puedo hablar de muchos temas el mismo día

nadie me ha dicho nada nadie

se trata de que este parlamento diga que se opone y que rechaza la creación de nuevas figuras impositivas o la inclusión de recargos sobre alguna de las actualmente en vigor para financiar la dependencia tal como recientemente planteó el antiguo consejero de empleo y políticas sociales del gobierno vasco puesto que

deberían tomarse en nuestra opinión medidas distintas que siguen sin ponerse en marcha como suprimir el gasto

como en el sector público societario priorizar correctamente

o luchar más contundentemente contra el fraude fiscal entre otras muchas es decir queremos que esta cámara se posicione en contra de unas declaraciones realizadas en un momento determinado por el antiguo consejero de empleo y políticas sociales yo entiendo que cuando un

en concreto plantea una propuesta concreta está hablando como consejero y también está hablando como miembro del gobierno vasco y por lo tanto

diga que no está de acuerdo con aquello que propuso independientemente de que haya

en las últimas semanas qué es lo que dijo el señor

allá por el mes de noviembre bien defendió un impuesto para garantizar el servicio de dependencia según los medios de comunicación y así fue se decía que no sea recatado en pedir un recargo impositivo o un impuesto específico para atender a la dependencia en el marco de una reforma fiscal que genere más recursos para el sistema de protección social se trataría por lo tanto de habilitar en euskadi una carga impositiva que garantice el futuro

sociales y que la dependencia pudiera ser contemplada como una contingencia de la seguridad social se mostró seguro de que la respuesta a su petición sería positiva si se preguntara a los ciudadanos si estarían dispuestos a pagar más impuestos para asegurar las pensiones o a atender mejor a la dependencia también dijo que el reto de futuro de las políticas sociales financiación y reiteró que con dinero público no se debe facilitar el acceso a la propiedad de la vivienda y además de esto que no se puede discutir un derecho subjetivo

algo tan sencillo como cuánto cuesta y quién lo paga esa es su propuesta esa fue su propuesta entendemos que no era una propuesta personal

personal sino que la hacía como consejero y como miembro del gobierno

parlamento diga que no está de acuerdo con esa propuesta qué era lo que en nuestra opinión pretendía trasladar

señor consejero con aquellas declaraciones y con algunas otras declaraciones que se han hecho también por parte de otros miembros del gobierno vasco o incluso por parte del propio

el estado del bienestar del que disfrutamos unas declaraciones que no son casuales sino que están perfectamente enmarcadas dentro de una estrategia y que pretenden vendernos la idea y vender esa idea a conjunto de la ciudadanía de que no pueden prestarse

de que no se pueden ampliar derechos que deben recortarse determinados servicios y que pueden justificarse por lo tanto determinados recortes sociales que ya ha impulsado este gobierno para finalmente poder cuadrar las cuentas y en nuestra opinión esto es una mentira no hace falta crear nuevos impuestos ni pedir ningún recargo impositivo para sostener el actual estado del bienestar o incluso

este planteamiento del señor consejero venía a cuento en relación con lo que se

de vivienda en relación al derecho subjetivo a la vivienda era una forma de decir que el gobierno vasco anunciaba que no había recursos suficientes para garantizar ese derecho subjetivo y ya digo en general para tratar de trasladar a la ciudadanía que no hay recursos suficientes para garantizar el estado del bienestar y que por lo tanto

los recortes sociales que se han impulsado y que seguramente habría que impulsar nuevos recortes sociales tenemos algún antecedente en relación a estas

algo parecido hace tres años e incluso el propio portavoz en este caso de la diputación foral de bizkaia vino a decir que habría que reflexionar sobre el modo de financiación existente de los servicios públicos esenciales y yo creo que esto se enmarca en una estrategia del partido nacionalista vasco y del gobierno para ya digo trasladar esa idea de que los recortes sociales son indispensables

no estamos de acuerdo en absoluto con esta posición estamos seguros pensamos al menos que los ciudadanos no ven con buenos ojos esta posibilidad y que lo que los ciudadanos se plantean es que se tomen otro tipo de medidas que se liberen recursos

instancia sostener el estado del bienestar mantener los servicios públicos o incluso ampliarlos y nosotros lo que décimos es lo que hemos venido diciendo

se pueden suprimir las embajadas se pueden reducir las partidas destinadas a la política lingüística más de ciento diez millónes de euros anuales se puede redimensionar la estructura de e i te be que nos cuesta ciento quince millónes de euros anuales se puede reformar el entramado institucional para hacerlo más ligero y más y más racional se pueden suprimir o reducir el ingente número de empresas públicas entes fundaciones que siguen existiendo por no hablar del dinero público que se va por las alcantarillas para acabar finalmente en manos de determinados amigos de algunos

forma en última instancia de corruptelas o directamente de corrupción ese es nuestro planteamiento no estamos de acuerdo con el planteamiento del consejero

esa idea de que los recortes sociales están justificados de que determinados derechos no se pueden ampliar y que por lo tanto antes de tomar ese tipo de medidas

que tomar para que en última instancia el dinero público se destine a lo que realmente importa al conjunto de la ciudadanía sistema vasco de protección social

estado de bienestar educación sanidad sí hay recursos lo que se trata de hacer es destinarlo a lo que realmente importa al conjunto de la ciudadanía

nos ha recomendado que pudiéramos retirar esta iniciativa porque

que salvo que se diga otra cosa esta es la posición del departamento y es la posición del gobierno vasco y queremos que este parlamento diga que no está de acuerdo en absoluto
con esa posición gracias eskerrik asko maneiro jauna

legealdi honetako lehen zerga politikako monografikoan bertan esan nuen lo primero que debemos preguntarnos es qué país queremos qué sociedad queremos

qué bienestar queremos para nuestros ciudadanos y ciudadanas y a partir de ahí construir un sistema fiscal que lo alimente y lo sustente un sistema

muchas gracias señora presidenta a nosotros también nos sorprendieron en su día las declaraciones no solo del señor aburto sino de otros miembros del gobierno y por eso también en su día hicimos las iniciativas que hicimos y evidentemente nos sorprendían mucho

a todos los ciudadanos para garantizar el estado de bienestar social y de ahí

y luego el pacto del pnv y el psoe al que nos sumamos intentando rebajar a las pequeñas rentas la subida que se les proponía es decir teóricamente aquí esto ya se ha hecho

por eso no es muy comprensible que el gobierno o alguien del gobierno o de la oposición

se esté planteando crear nuevos impuestos para lo mismo porque o era mentira la subida de impuestos

y en esta administración es que aquí todo el mundo reflexiona sobre cómo les cobramos más a los ciudadanos y cómo pagan más impuestos los ciudadanos

cómo gestionamos mejor o cómo gastamos menos y damos más servicios a los ciudadanos y me voy a explicar porque ya que estamos hablando de bienestar social pues en fin el señor aburto que proponía eso no es precisamente el campeón de la gestión no es precisamente

del dinero público y por sus mismos datos y por sus mismas cifras

que se podía haber ahorrado mucho dinero en la rgi

y aplicarlo a otras cosas aquí no hace falta cobrar más a nadie ya había dinero y luego tenemos otra proposición

del mismo ex consejero en el cual los inspectores de trabajo de repente se han quedado reducidos a la mitad ahora eso sí

en el que afecta a los ciudadanos las ayudas a las familias las ayudas a la conciliación de la vida familiar y laboral pero sin embargo su gasto corriente se ha incrementado como en este presupuesto que tenemos ahora este presupuesto contaba con más de cuatrocientos millónes de euros respecto al ejercicio pasado dónde van porque nosotros ya lo planteamos aquí cuando tuvimos el debate de los presupuestos a gasto corriente del propio gobierno

para incentivar el empleo ni una medida para crear riqueza ni una medida para beneficiar a los ciudadanos en algún ámbito de las competencias

sabemos que hay muchos sitios donde se puede ajustar lo llamaban unos recortar lo llamaban otros gestionar mejor

pero es evidente que este gobierno tiene muchos sitios donde puede ahorrar mucho dinero y que los ciudadanos no se iban ni a enterar de que había desaparecido

esa gestión o ese acto en el que este gobierno se gastaba el dinero

ya es cuestión de decidir y de decisión y este gobierno lleva ya más de dos años de gobierno siguiendo la inercia de seguimos elevando la deuda seguimos elevando la deuda recortamos servicios y derechos de los ciudadanos pero nuestro entramado sigue igual y ese es el problema de este gobierno que no toma decisiones que beneficien a los ciudadanos

o vamos a poner más recargos pues lo que está diciendo es que aquella famosa subida de impuestos no servía por lo menos para lo que pretendía ahora

luego resulta que no es para la finalidad sino para financiar otras cosas y evidentemente nosotros no estamos por la labor estamos por la labor

y contra todo tipo de fraude para nosotros es igual un fraude que otro nos da igual quién defraude

es nuestro dinero el dinero de los ciudadanos y de eso es de lo que tiene que responder el gobierno

perfectamente razonable y decía que no entendía la enmienda de bildu porque no entendía el primer punto porque claro que nos diga que hay que plantear un nuevo fiscal integral que se debe basar en la equidad las rentas diferentes no pagan igual la progresividad el que tiene más pague más pensaba que eso ya estaba que eso ya lo tenía gipuzkoa no tiene

pues miren donde nosotros hemos apoyado o hemos votado algún impuesto eso ocurre eso ocurre en españa

y con perdón ocurre en gipuzkoa usted podrá subirlo más bajarlo más pero hasta donde yo recuerdo ustedes ya plantearon lo que plantearon

todo el sistema fiscal no conozco ningún sitio del mundo que tenga las competencias fiscales que tenemos nosotros

ningún estado federal ningún estado confederal no conozco ninguno hombre un estado independiente sí

si su planteamiento es ese pues díganos es que queremos la independencia vale

ni de bienestar social ni de subida de impuestos por eso le digo que no entendía muy bien su propuesta eskerrik asko

presidenta señorías upyd el señor maneiro hoy nos trae una que se le podría llamar de carácter preventivo se trata de evitar la

la penosidad y la toxicidad por eso

se va a posicionar sobre unas declaraciones

y que no sé si las declaraciones se quedaron en el lugar donde en estos momentos está quien fue el consejero o si el gobierno vaco tiene la intención de resucitarlas pero bueno en principio

de querer resucitar esas declaraciones y lo que significan políticamente por eso estamos ante una pnl de carácter absolutamente preventivo

votar a favor porque al margen de que sea preventiva lo que se sustancia estamos de acuerdo que no haya un impuesto específico

una política social en este caso como es la dependencia estamos de acuerdo y por eso el acto de testimonio que podemos hacer en este parlamento

en cualquier caso hace año y medio aproximadamente se propuso una reforma fiscal hubo un debate parlamentario

se podría haber planteado por algún grupo el que hubiera un impuesto específico para una política social específica nadie tampoco lo planteó

no sé hasta qué punto estas declaraciones son declaraciones muy pensadas muy asumidas que formen parte del ideario político de un grupo

estamos aquí y forma parte del orden del día cumpliremos con nuestro trabajo responderemos y diremos aquellas cosas que nos parecen oportunas

el pleno de este parlamento ha empezado con un primer punto que es el del fraude fiscal hemos hablado

billones de euros defraudados con una ingeniería fiscal defraudados socialmente al conjunto de la ciudadanía europea escamoteados y efectivamente cuando se plantea de dónde se puede pagar los servicios públicos está muy claro

con la fiscalidad decente con la fiscalidad legal con la fiscalidad que se aprueban en las leyes

la fiscalidad a la carta o cualquier otra artimaña como la que han usado desde luxemburgo o desde otros países

por lo tanto hay recursos lo público se puede pagar señor damborenea lo público se puede pagar lo público tiene recursos

hay algunos que se lo llevan y que no hay todavía en estos momentos los instrumentos suficientes para que los que se llevan lo tengan que devolver y además no se lo puedan llevar nunca más

hay recursos públicos hay que cogerlos donde están con nuestra legislación actual se puede ir a por ellos tenemos una fiscalidad suficiente para tener

y para atender en suficiencia todas las políticas sociales que se están dando y además para recomponer aquellos recortes copagos y repagos que injustamente se han aplicado por lo tanto apoyaremos la

legez besteko proposamenaren atalik garrantzitsuena esta no es la parte sustancial de la propuesta pero la incluye usted en la proposición eta

esas medidas que usted propone como usted sabe porque una y mil veces se lo hemos dicho y se lo hemos explicado con datos concretos se han adoptado por el gobierno vasco

que en su proyecto ideológico no tienen cabida pero es que su proyecto

no tiene el amparo y la protección de la sociedad no es el que la sociedad vasca ha elegido que sea el que se ejecute

de su proyecto ideológico pero no es el de este gobierno vasco pero las partidas ineficientes ya

se han tomado medidas y se han dio reduciendo beste alde batetik aipatzen dugu

etorkizunerako gogoeta bat planteatzea y en el horizonte

de la población y del consiguiente aumento de las situaciones de dependencia se requerirán recursos públicos muy superiores a los actuales

y lo que hizo fue plantear una reflexión y alternativas que a su juicio serían posibles aburto dijo en concreto otro reto del futuro de las políticas sociales es el de la financiación del sistema a futuro

no hablo ni de hoy ni de este año ni del año que viene estoy hablando de un futuro

alcancemos esa situación de dependencia hay que ir reflexionando y pensando

que todos nosotros también conocemos tal vez no con la profundidad que aburto por los datos de los que dispone pueda

hemos aprobado esa reforma profunda en las juntas generales de los territorios históricos a la que antes se ha mencionado con vocación de estabilidad por tanto

ninguna modificación en este ámbito ni tampoco este es el sitio en su caso cuando proceda para hacerlo pero todas las propuestas y reflexiones

analizadas su viabilidad jurídica y en el momento que vuelva a plantearse la necesidad de realizar otra reforma fiscal deberían negociarse para lograr un amplio consenso político como la reforma fiscal que ahora se ha realizado ha tenido

nos abstendremos porque ahora que acabamos de aprobar esa reforma como decíamos consideramos que no es el momento oportuno tampoco este es el sitio oportuno pero

tipo resultan absolutamente interesantes para que cuando tengamos que tomar las decisiones oportunas la reflexión se haya hecho con exhaustividad

con responsabilidad y exento de demagogia y populismo que es por donde se está desarrollando este debate eskerrik asko eskerrik asko gorospe andrea

sí gracias presidenta gracias a los grupos que han mostrado su apoyo a esta iniciativa

a la portavoz del grupo nacionalistas vascos por permitirme intervenir para defender esta iniciativa a pesar de que únicamente recibimos

soy solamente uno entre setenta y cinco parlamentarios por cierto el mismo porcentaje representa upyd en esta cámara que lo que representa el partido nacionalista vasco en el congreso de los diputados y no por eso

de decir que upyd es solamente es uno que solamente tenemos

del partido nacionalista vasco de decidir abstenerse ante esta iniciativa de upyd

dice que no está de acuerdo con aquellas declaraciones y aquella propuesta

adelante esta iniciativa vamos a ver yo no me considero

pero yo creo que las declaraciones del señor aburto no son o no fueron unas simples declaraciones

a futuro o cosa parecida es una estrategia es la habitual estrategia que llevan a cabo aquellos partidos políticos y aquellos gobiernos justificar los recortes sociales que han impulsado o que quieren justificar próximos recortes sociales o que quieren justificar la negativa a tomar en consideración determinados nuevos derechos subjetivos que pueda aprobar esta cámara creo que no son por lo tanto unas simples declaraciones o unas reflexiones es una estrategia para tratar de vender a la ciudadanía

antes de que no hay dinero suficiente y por lo tanto los recortes sociales están justificados es una iniciativa de carácter preventivo sí

ni con esa estrategia del gobierno vasco yo creo que la mayoría de las iniciativas que se presentan en esta cámara son de carácter preventivo para instar al gobierno a que no haga determinada cosa que se sospecha puede hacer por lo tanto

de denuncia efectivamente hubo una reforma fiscal consecuencia de la cual hubo un incremento de los impuestos a la mayor parte

ya se aprobó e incluso a nosotros nos pareció bien no solamente nos pareció bien que incluso nos pareció incluso corta y seguro que hay determinadas reformas fiscales

ni a dar por bueno a día de hoy es que el gobierno trate de vendernos la idea de que hay que incrementar los impuestos a la ciudadanía para poder sostener el estado del bienestar eso es una mentira es falso no hace falta incrementar los impuestos a la ciudadanía para sostener el estado del bienestar

la estrategia del gobierno esa fue la idea del consejero cuando planteó aquella idea no fue una reflexión personal fue una estrategia hay que subir impuestos

y nosotros no estamos en absoluto de acuerdo y parece ser que el partido nacionalista vasco tampoco está de acuerdo el consejero pretendía iniciar para que se pueda producir cuanto antes una reforma fiscal que tenga como consecuencia el incremento de los impuestos no no pretendía eso tampoco

a impulsar la reforma fiscal última no pretendía incrementar impuestos

recortes sociales que están justificados y otros nuevos pueden producirse esa es la idea y por eso a mí no me parece un tema menor sino que me parece un asunto relevante y en los últimos tiempos determinados representantes políticos que están a favor de los recortes sociales vienen a decirnos todos los días a todas horas hay que reflexionar sobre el estado del bienestar

otro tipo de cuestiones que nosotros ponemos encima de la mesa por qué no se reflexiona sobre eso por qué no se reflexiona sobre la grasa en la administración que sigue existiendo a día de hoy por qué no se reflexiona sobre la política lingüística que nos cuesta ciento quince millónes de euros anuales

por qué no se reflexiona en relación a lo que nos cuesta e i te be y para qué sirven esos ciento quince millónes de euros anuales o las delegaciones vascas o el entramado institucional

por qué no se reflexiona acerca de las ayudas al deporte profesional que nos cuesta también una gran cantidad de dinero sobre todo eso no hay que reflexionar sobre

y es lo que nosotros planteamos por lo tanto lo que planteó el consejero no lo compartimos hay que impulsar otro tipo de

para ahorrarnos dinero y desde luego para sostener el estado del bienestar porque es lo prioritario ese era el planteamiento de nuestra iniciativa gracias por lo demás a los grupos que van a votar

sí muy brevemente desde el escaño

era a futuro pero recién aprobada la subida de impuestos en este país para garantizar esos servicios sociales

y a nosotros nos da igual que se hable de recargo de nuevos impuestos o lo quieran llamar como lo quieran sabemos que al final siempre pagan los mismos que son los ciudadanos de a píe

y cada vez que se plantea por alguien en este país o fuera de este país que hay que poner un recargo que los más ricos van a pagar que tal no sé qué pues ya sabemos que eso es mentira y que eso no es así que siempre son los mismos los que pagamos en este país y por lo tanto como he dicho antes este gobierno no sé si tiene mucha grasa en muchos sitios desde luego michelines unos cuantos

de gasto que los ciudadanos si se suprime o se rebaja

cuál es el apoyo que tiene su partido no estoy diciendo que la iniciativa no sea respetable en absoluto creo que este debate lo hemos tenido más veces es muy respetable pero viene bien recordarle

claro lo único que hago es recordarle cuál es el apoyo

ideológico tiene entonces lo razonable es

es el que se ejecute es una estrategia decía en absoluto es ninguna estrategia a mí lo que me hace muchísima gracia señor maneiro es que habiendo estado aquí el consejero aburto él mismo ha explicado qué

y dejándolo bien claro venga usted aquí a hacer de intérprete de aburto a decirnos que lo que dijo no es lo que dijo y a decirnos qué es lo que efectivamente quiso decir

que debemos ir dándole unas cuantas vueltas y desde luego que en ningún caso era una propuesta concreta para aplicarse de forma inmediata eskerrik asko

lo leo ah no has leído pues no sé que estabas haciendo hirugarren puntua

gracias señora presidenta señorías presento esta iniciativa va a ser de manera breve les advierto que no se vayan muy lejos porque lo queremos hacer rápido tenemos un amplio

lo importante es el acuerdo y no lo que vayamos a decir en este caso pero sí centrar la iniciativa y decir que hace referencia a la necesidad de aplicar

señorías coincidiremos todos en que la energía más limpia la energía más económica es la que no se consume esto nos mueve al grupo popular a presentar esta iniciativa haciendo hincapié en la necesidad de aplicar

el consumo energético medidas que contribuyan a reducir el coste energético aplicando e introduciendo tecnologías más eficientes medidas para reducir la dependencia energética y también para reducir el impacto medioambiental

en esose centra nuestra iniciativa y además queremos hacer una mención a las disposiciones y directrices de la unión europea directiva europea dos mil diez donde se fijan los objetivos y propone las medidas que los estados miembros deben de poner en práctica para conseguir el objetivo dos mil veinte y en ese sentido debemos de contribuir la comunidad autónoma en este caso

y hemos conseguido con la aportación de los distintos grupos y también la incorporación

que el parlamento vasco inste al gobierno vasco a que presente en este periodo de sesiones un decreto de sostenibilidad energética que incluya la obligación de un diagnóstico y auditoria del consumo energético en la administración pública vasca

los objetivos y actuaciones para reducir el consumo energético y el segundo punto del acuerdo que hemos llegado es que el parlamento vasco insta al gobierno vasco

para las administraciones públicas y su sector público en el ámbito de la comunidad autónoma de euskadi decir que es una ley que no estaba en el calendario pero que el gobierno se ha comprometido a traerla porque dice tener avanzado un trabajo

ambiciosa que estaremos muy atentos pero de entrada nos creemos el compromiso del gobierno y por lo tanto creemos que es una buena

medidas y criterios que esta comunidad autónoma va a poner en práctica o en marcha para contribuir al ahorro energético que la unión

la sostenibilidad energética ha de ser entendida como el uso racional de la energía de manera que no se ponga en riesgo el desarrollo de generaciones futuras

la equidad social y la reducción del impacto ambiental alcanzar ese equilibrio que a priori podría parecer sencillo requiere sobre todo gran voluntad política la sostenibilidad energética es de necesaria implantación en el sector primario en el industrial y en el sector servicios así como en los hogares y por supuesto

en este sentido euskadi ha dado diferentes pasos como la implantación y desarrollo de distintos programas el programa de ayudas a inversiones en eficiencia energética en ayuntamientos

mediante contratos con empresas de servicios energéticos todos estos programas contribuyen a alcanzar los objetivos marcados en la estrategia energética de euskadi dos mil veinte entre ellos principalmente el uno y el cuatro son básicos para lograr la sostenibilidad energética

y la sostenibilidad energética ya en dos mil once se tomó una medida casi idéntica a la que hoy se plantea el gobierno vasco aprobó la reducción

en cincuenta edificios públicos cuyo consumo de energía fuese superior a

esto se pretendía realizar con la colaboración del ente vasco de la energía y el ente público del departamento

fueron incluidas como posibles unidades de actuación hospitales ambulatorios edificios del gobierno vasco campus de la upv e i te be la academia de arkaute

de erandio comisarias institutos museos juzgados promociones de vivienda de alquiler del gobierno vasco

plan era la identificación mediante diagnóstico y auditorías energéticas del potencial de ahorro e instalación

en estos edificios aunque ciertamente desconocemos el resultado obtenido con este plan creo que queda patente que existe una clara voluntad de alcanzar en euskadi

incluyendo por supuesto la administración pública vasca compartíamos compartimos lo expuesto en la justificación de la iniciativa al respecto de la necesidad de implantar

e incluso auditorias energéticas tanto para reducir el consumo como para estudiar el posible uso de energías renovables sin embargo considerábamos que sin ese diagnóstico previo

y lo correcto sería hablar de alcanzar el máximo porcentaje de ahorro posible en términos de eficacia lo mismo a la hora de determinar qué edificios deberían ser incluidos por qué aquellos con un consumo superior

deberían ser incluidos en nuestra opinión todos aquellos en los que fuese posible reducir el consumo sin afectar a la actividad

es por esa razón que también hemos considerado necesario incluir

y de los trabajadores de la administración pública vasca y su sector público sobre la importancia del ahorro energético como parte de una estrategia integral en la búsqueda de la sostenibilidad

nuestra enmienda en la que proponíamos instar al gobierno a impulsar un plan que tenga como objetivo

en la administración pública vasca y también en el sector público y decíamos que dicho plan debería constar

se llevaría a cabo un diagnóstico y una auditoría del consumo energético que se produce en la administración y su sector público que debería estar finalizado y ser presentado en el parlamento

y por otro lado una segunda fase de implantación y puesta en marcha de las medidas recogidas en ese plan en todo caso sí hemos llegado a una transaccional que no sé si creérmela demasiado yo espero que efectivamente se lleve a cabo porque lo que se propone la ley de sostenibilidad energética para las administraciones públicas y su sector público

recogida en el calendario legislativo y además sabemos qué es lo que ha pasado con el calendario legislativo que se ha incumplido en un porcentaje altísimo

otras se han presentado tarde por eso nuestra extrañeza

propusiera que el gobierno planteara una ley de sostenibilidad energética y lo planteara como enmienda daba la sensación de que a la vista

una ley en estos términos bueno definitivamente lo que se propone es que se una ley de sostenibilidad energética para las administraciones públicas y su sector público a nosotros nos parece bien nos parece bien lo que se recoge en esa transaccional y esperamos
lógicamente que se lleve a cabo gracias eskerrik asko maneiro jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria rojo andrea zurea da hitza

gracias presidenta desde el escaño únicamente para decir que votaremos a favor de la enmienda transaccional que hemos llegado todos los grupos firmantes

altamente consumidor de energía sin apenas recursos naturales y con una fuerte dependencia del exterior el ahorro y la eficiencia se convierten en nuestro mayor

relativa a la eficiencia energética establece el marco adecuado para conseguir el veinte por ciento de ahorro de energía en dos mil veinte fijando exigencias de carácter mínimo que pueden ser mejoradas por los estados miembros

a jugar como tantas otras veces en el pasado un papel pionero en la aplicación de soluciones innovadoras de ahorro eficiencia energética y promoción de energías renovables competitivas en esta línea y coincidiendo con el programa de gobierno en su compromiso por el empleo

en el eje de una estrategia energética a favor de las energías renovables y en la iniciativa de potenciar el ahorro y la eficiencia energética en edificios y viviendas

y sensibilizando en el consumo responsable de la energía a la ciudadanía en general

por el que se regula la certificación de la eficiencia energética de los edificios así como la orden por la que se regula el control y el registro de los certificados de eficiencia energética procede por tanto en esta labor de pilotaje seguir dando ejemplo como administración pública en ahorro eficiencia energética y promoción de energías renovables competitivas

transaccional para la presentación de este decreto que pueda dar ejemplo al resto de administraciones públicas del país vasco y lógicamente señor maneiro no sería posible si no se tiene trabajada esa ley de sostenibilidad hacer el planteamiento que hemos hecho entonces

y lógicamente regulada de trasladar al resto de administraciones públicas este trabajo de sostenibilidad es a través de esta ley y creemos que es eficiente

tristemente lo que creo que a usted le ha dolido es que esto no haya salido de usted porque vamos el que ir avanzando pasos en la eficiencia energética y en esto usted se abstenga porque dice no es que lo firma el pnv y el pp pues bienvenido a este mundo señor eskerrik asko
eskerrik asko carro jauna maeztu jauna zurea da hitza sí sin carreras alocadas hasta el estrado simplemente para decir

que han aprobado la reforma energética es decir quienes están aprobando el modelo energético actual en el estado español

una paradoja aprueban ustedes aquí una medida para la eficiencia y el ahorro energético en los edificios públicos pero a la vez con la reforma energética que ustedes han votado a favor en madrid impiden que esos edificios puedan tener placas puedan estar autoconsumiendo y aquello que sobra que es lo más eficiente que existe en estos momentos y no porque han puesto un impuesto específico el peaje de respaldo para poder hacer eso

acaban de firmar a favor de la eficiencia y en contra del autoconsumo eskerrik asko maeztu jauna